presidenta señorías ante esta capacidad de convocatoria que suele tener la sesión de la tarde y sabiendo desde el primer punto tratemos un asunto de

para la sociedad vasca y para la humanidad que es

reglas y controles para que la política se pueda ejercer de la mejor manera posible esta pnl que presentamos hace ya

creo que exactamente fue el siete de mayo de este año lo que pretendía era reclamar del gobierno la presentación de la liquidación del presupuesto del dos mil trece y establecer también un criterio para la presentación

para la presentación de los presupuestos de los años siguientes en la gestación de esta

ha habido esa presentación de la liquidación del presupuesto del año dos mil trece y por lo tanto la propuesta que traíamos de dos puntos el primero ya no tiene ningún sentido pero sigue teniendo el sentido el siguiente que es el de

que los dos primeros meses del año se presente esta liquidación

ha habido otros criterios exactamente uno de ellos ha sido del partido nacionalista vasco

nos ha parecido razonable porque efectivamente enero y febrero son dos meses

haciendo pagos a consecuencia del presupuesto del año anterior

bastante razonable y prudencial que en el mes de marzo

pueda estar presentada por lo tanto se trata de que la política tenga reglas que la política tenga

y de los acuerdos que tiene el gobierno y que la oposición

hacer ese papel de impulso y de control que tiene que hacer solo el gobierno como ven no tiene mayor misterio

vista la concurrencia y el momento si tuviera más misterio sería un problema por lo tanto

sencillo para resolverlo pronto y para dar tiempo

votaré a favor de la transaccional que han firmado gracias eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari veo que se mueve rápido hoy este es

un a la tarde a este tema a

el señor prieto y este es un tema en el que a nuestro grupo hace ya muchos años le preocupaba y que las liquidaciones de los presupuestos

que se adelantara al treinta y uno de mayo modificando la ley y hoy el partido socialista ha firmado

que sustituye la palabra avance por liquidación provisional entonces como estamos de acuerdo

la liquidación definitiva estará a la espera de que venga mucha documentación y que hace falta saber los contratos de verdad que ha habido

o de una liquidación provisional es decir no definitiva y por eso estamos hablando en tres meses en dos meses o en un mes pues tampoco tiene tanta importancia

ese avance de cierre o esa liquidación provisional como le queramos llamar

venga en febrero o venga en marzo será más o menos provisional

que es lo que aquí se ha acordado que venga una liquidación provisional y por lo tanto nosotros aquí

sirve de gran cosa una liquidación provisional y que al mes siguiente el gobierno te diga que es lo contrario de lo que ha mandado digo a efectos de para lo que

nos puede interesar conocer exactamente cuál ha sido el gasto y cuáles han sido las partidas del ejercicio anterior porque esa es

de este parlamento saber en qué se ha gastado el dinero el gobierno vasco

y es evidente que eso solo se sabe cuando se ha gastado porque las modificaciones presupuestarias a lo largo del año mes a mes y aquí llegan cuando llegan que es evidente que llegan más tarde de cuando se ha producido la información que nos llega un mes o dos meses después

gasto real del gobierno sea el que sea se produce cuando viene la liquidación

es muy importante conocerlo porque además

si las prioridades del gobierno han sido las que inicialmente estaban previstas en el presupuesto teóricamente

esas modificaciones presupuestarias han operado por lo tanto a nosotros en el fondo nos daba igual que fuera dos meses tres meses o un mes

es para dar una idea hombre en el noventa y cinco o noventa y siete por ciento del gasto del gobierno vasco

es interesante y yo nunca he entendido la excusa

desde este gobierno y en este parlamento

vemos cómo bancos que manejan diez veces más quince veces más

que teóricamente gasta el gobierno vasco prácticamente están dándolo a cuenta de resultados en el mes de febrero o sea no están esperando cinco meses para ver si todavía les quedan gastos por ahí o no les quedan gastos

compañías incluso de este país para el mes de febrero

sino que además las han explicado y las han facilitado a los ciudadanos a los accionistas a los medios de comunicación y todos nos hemos enterado

que tanto que se habla del sistema informático y de los nuevos medios que tenemos en fin el día uno de enero lo lógico es que si das a una tecla por lo menos provisionalmente este gobierno cualquier gobierno cualquier ayuntamiento cualquier diputación todos los gobiernos dando una tecla más o menos les tiene que salir cuál es la liquidación provisional el avance del cierre

algún contrato que llega tarde o algún gasto que llega tarde pero que puede afectar qué

pero siempre nos ha extrañado en este parlamento la dificultad de todos los gobiernos del signo que sean que han tenido

facilitar esos datos que son los que al final nos dicen en qué nos hemos gastado el dinero de los vascos

que probablemente sea el más importante desde luego la democracia nace y surge en la edad media para el control del dinero para que los reyes no se gastaran el dinero en lo que quisieran sino que rindieran cuentas de

y lo que parece curioso o por lo menos extraño es que sigamos teniendo reticencias

repito que me da igual marzo febrero o enero es decir a que sigamos poniendo excusas de que es que es muy complicado decir exactamente cuánto nos hemos gastado o en qué nos hemos gastado el dinero no yo creo que es muy fácil en saber en qué

prácticamente el día uno no que es fiesta pero el día dos si quieren aprietan el botón y saben

y yo creo que cuando se habla de transparencia digamos que esta es una de las principales medidas en las cuales todos los gobiernos debieran tener especial cuidado

aurrekontuen inguruan norma foral de presupuestos

de la ejecución del presupuesto y de la situación financiera esta información se remitirá dentro del mes siguiente al que hace referencia cada informe

proiektuan egin eta martxan jan ditzatela la convocatoria de ayudas para las acciones locales

dentro del programa de reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis en el marco del acuerdo interinstitucional firmado entre el gobierno vasco diputaciones forales y eudel y el objetivo específico de este acuerdo y del programa de reactivación del empleo al que he hecho referencia

el diseño y ejecución de planes específicos de promoción de empleo en el ámbito local

el objetivo final por tanto es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas que puedan estar inscritas en lanbide servicio vasco de empleo

cantidad pequeña hablamos de una cantidad importante y los ayuntamientos afectados son cincuenta y uno ayuntamientos afectados

resuelta las ayudas previstas en esta convocatoria y por lo tanto no había llegado el dinero que esperaban los

habían realizados sus propios planes de empleo a raíz de esta convocatoria

ayudas previstas en esta convocatoria específica ya que los ayuntamientos no podían poner en marcha sus respectivos

por cierto los ayuntamientos de la comunidad autónoma del país vasco de euskadi presentaron sus proyectos en los plazos marcados en la propia resolución allá por el mes de noviembre es decir tuvieron un mes para presentar sus respectivos planes proyectos de empleo

del dos mil catorce el veintidós después de presentada esta iniciativa más denunciar la oposición el que no se liberaban los fondos previstos los veinte millónes de euros

los cuatro millónes de euros restantes hasta llegar a los veinte millónes de euros es decir el veinte por ciento quedan retenidos hasta que los ayuntamientos certifiquen la ejecución de los programas subvencionados

con retraso con meses de retraso y el plazo se prorrogó hasta el treinta y uno de mayo del año siguiente del dos mil quince

tarde se han habilitado los fondos de los que los ayuntamientos

en marcha como decía sus respectivos planes de empleo y por eso hemos considerado conveniente en el acuerdo que van a apoyar los grupos con representación en esta cámara por lo menos una inmensa mayoría no sé si el grupo con

acuerdo el grupo que apoya al gobierno pero se trata de poner otra vez

de este gobierno y aprovechando que está el lehendakari aquí lo vuelvo a reiterar el tema

aprobar resoluciones con convocatorias concretas para impulsar diferentes planes en este caso planes específicos en el ámbito local que luego no se doten

para su ejecución por lo tanto ponemos nuevamente en una materia sensible en una materia absolutamente prioritaria como decía deberes a este gobierno y le instamos a que proceda a la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo con cargo al ejercicio dos mil catorce antes de finalizar el presente período de sesiones

hemos alargado hasta el año que viene el plazo hasta el dos mil quince

se agilice y por lo tanto se pueda proceder a la convocatoria antes de finalizar el presente período de sesiones pero también instamos al gobierno vasco obviamente una vez cumplido este primer punto a que

en cuenta que la anterior se ha prorrogado hasta el treinta y uno de mayo de dos mil quince y también instamos a que el gobierno vasco tenga en cuenta a la hora

las solicitudes que se tengan en cuenta la incidencia de la economía local y comarca según las necesidades y características de la zona

efectivamente este debate se ha sustanciado hace quince días

en el marco de proyectos locales en aquel entonces se hizo también una serie de críticas y reproches a la falta de diligencia

sobre estos proyectos sobre estos programas por lo tanto no voy a reproducirlos

además el gobierno había reconocido en su momento efectivamente ese retraso se disculpó por ello por lo tanto creo que reiterar lo dicho entonces pues sería un poco redundante en todo caso la transacción que hemos alcanzado con el partido popular en el propósito y el ánimo del partido socialista

pero sí hemos venido viendo que algunas de estas actividades de estas acciones

que no se corresponde con la urgencia de los tiempos con las necesidades que plantea la sociedad y por lo tanto queremos imprimirle ese impulso

entendemos que las convocatorias de este ejercicio deben hacerse ya

constatar es que el tiempo que toma el gobierno para hacer estas cosas es un tiempo más o menos amplio y que luego esas convocatorias tienen unos plazos

y entendemos que para que puedan tener una mejor acogida para que puedan digamos ser susceptibles de suscribirse por más actores es preciso que

y que el anuncio de la misma sea cuanto antes se plantea que efectivamente esa convocatoria se ejecute a treinta de septiembre del año dos mil quince precisamente para evitar

de empleo local que se planteaban del dos mil trece que se van a ejecutar hasta el treinta y uno de mayo de dos mil quince efectivamente para que no se solapen acciones de esa naturaleza se vaya

la razón que nos anima a suscribir este acuerdo y nada más eskerrik asko itxaso jauna

orain aurkeztu dutena esperábamos una enmienda transaccional recogiendo lo que los tres grupos solicitaban pero una vez más aprovechando

que una vez más no aparece en la iniciativa original ni

enplegagarritasuna hobetzea deialdi honen helburua desde el inicio de la presente legislatura

ha marcado como primer eje de su labor el empleo la reactivación económica el gobierno en su conjunto y el departamento de empleo y políticas sociales en particular han ido aprobando distintos planes con sus correspondientes dotaciones presupuestarias

que es la que generará empleo en última instancia y que aunque de manera incipiente todavía parece que empieza a reflejar datos esperanzadores

esta convocatoria pretende continuar el camino iniciado con la orden de nueve de mayo de dos mil doce de la anterior consejera de empleo y asuntos sociales señora zabaleta

pero reforzada y mejorada muy sustancialmente para atender a las necesidades locales de empleo de cada ámbito territorial y especialmente a aquellos

que los índices de desempleo son más elevados creemos necesario reforzar la cooperación interinstitucional en materia de empleo

estarán de acuerdo conmigo siendo uno de los ejes estratégicos además recogido en el programa de reactivación económica de reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis y así lo hemos hecho con esta orden desde el momento de su elaboración se persigue reforzar la dimensión local de la política de empleo en euskadi definiendo

local además persigue fomentar la cohesión territorial

hacía referencia a la misma mediante acuerdos que permitan compartir objetivos definir compromisos y criterios de actuación con los agentes locales teniendo presente que existen en euskadi zonas donde el desempleo es mayor por lo que la distribución del presupuesto entre las diversas comarcas y municipios se ha llevado a cabo

antes de que finalizara el plazo de enmiendas de la iniciativa el día siete de mayo ya

la orden de pago es del día veinticuatro de abril de dos mil catorce y la transferencia del día veintinueve del mismo mes y año

aburto en varias comparecencias y preguntas que se le han hecho al respecto incluso aquí en el pleno que la resolución se ha prolongado en el tiempo pero quedémonos con lo positivo las cantidades han sido transferidas e insisto

hace casi dos meses reiteramos la totalidad del primer pago y todas las entidades locales beneficiarias han recibido la cantidad correspondiente

beraz eskatzen duzuena gure ustetan hasieratik betetzen ari da eusko jaurlaritza respecto a la enmienda presentada por el partido socialista también se está cumpliendo a día de hoy lo que ustedes solicitan señor itxaso por resolución de fecha de dieciséis de mayo de dos mil catorce del director general de lanbide se procede a la publicación de la modificación de la convocatoria de ayudas locales

estando pendiente de resolución la convocatoria en el ejercicio dos mil trece

y la imposibilidad de su ejecución en el plazo señalado de modo que con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones subvencionadas se hace necesario modificar la fecha de ejecución de los proyectos para ampliarla hasta el treinta y uno de mayo de dos mil quince

en el punto segundo de su enmienda la ampliación del plazo fue publicada en el boletín oficial del país vasco de diecinueve de mayo pasado hace exactamente hoy un mes por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa original con las enmiendas presentadas tanto por el partido socialista como por eh bildu pero

y reconociendo que la labor de la oposición es poner deberes al gobierno

porque estábamos hablando del dos mil trece y no del dos mil catorce pero bueno como aquí todo vale y utilizando artes

no muy rigurosas vamos a decir han aprovechado y ponen deberes para el dos mil catorce

de las enmiendas que ustedes presentaron señores socialistas y señores de eh bildu eskerrik asko

de la labor de este gobierno es el empleo puede ser el primer eje sí le hemos oído en reiteradas ocasiones hablar al lehendakari en esta cuestión y anunciar como

a bombo y platillo al propio consejero pero luego si la dotación económica necesaria para que los ayuntamientos pongan en marcha los planes de empleo correspondientes

a las ayudas para que se pongan en marcha no llega el dinero pues no hacemos nada y por lo tanto creo que este gobierno pues en ese sentido no ha estado diligente y ha habido que recordarle

bai bai orain bai bueno las cosas de no estar acostumbrada a hablar pues por abreviar bueno decía que en cualquier caso

viendo el recorrido que está teniendo este gobierno con los diferentes planes que tienen que ver con el impulso del empleo en relación en este caso a planes locales de empleo y en relación a planes del emprendimiento como tuvimos ocasión de debatir hace dos semanas pues este gobierno no ha estado diligente no ha estado a la altura de las circunstancias y por eso vemos conveniente ponerle deberes para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido

ba akordio zabal bat egongo dela y lamentar también que la señora arregi a parte de dar su en su intervención no hemos podido oportunidad de saber cuál va a ser su voto

al menos este parlamentario entiende que lo que se propone es un debate un debate sobre la cuestión que contenga la iniciativa la misma lo que plantea es

pero los debates se sabe como empiezan y no como acaban en el procedimiento que está aquí establecido el momento de presentar las enmiendas es un disparo de aproximación y luego se corrige se corrige el alza bien arriba o abajo en este caso el alza ha elevado el nivel de exigencia

a un acuerdo con el partido popular y terminan las cosas

pero es que cuando se establece la propuesta de un debate están abiertas todas las posibilidades luego va a depender efectivamente de la proximidad de la distancia que pueda haber entre unas posiciones y otras para alcanzar los acuerdos a veces no se alcanzan acuerdos a veces decaen las propuestas y otras veces salen adelante con un resultado no esperado creo que esas son

los debates en esta casa por lo tanto creo que eso no puede ser en modo alguno motivo de reproche lo que está planteando la enmienda de transacción básicamente es

pero no creo que eso pueda ser como dice usted malas artes ni nada por el estilo es simplemente

en que ningún grupo hablaba del dos mil catorce en sus iniciativas originales garrido andreak

el ánimo no es poner deberes al gobierno ha dicho pues menos mal porque estábamos hablando de una iniciativa muy concreta respecto a una resolución muy concreta

como incluso corregida y apareció en el boletín de hace un mes y

sí aprovechando sí pero está claro que también existen unas normas de juego cuando decidimos jugar al parchís sabemos las normas que tenemos y aquí

que para nada hablaban de dos mil catorce si a mí me parece bien que la labor de la oposición es poner deberes al gobierno

o comparecencias o pregunta al consejero consejera lo que quieran pero no vale aprovechando presentar una iniciativa y cuando se dice y se sabe que ya está cumplida

hasta el dos mil veinticinco por qué no por qué no han aprovechado ya el viaje total como las normas de juego valen para todo y son

pues eso desde luego no es actuar con rigor y no nos parece nada adecuado no vamos a apoyar su iniciativa la transaccional